laguntzak como decía la historia se repite volvemos a traer

parlamento el debate de una iniciativa en relación a los planes locales de empleo por la falta de diligencia del gobierno vasco en relación a estos planes

de las mismas el año pasado a través de una iniciativa

de la resolución de la convocatoria publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece para las acciones locales de promoción de empleo la falta de agilidad

como vimos con la que acabo de señalar ocasionó un claro perjuicio a los ayuntamientos el propio ex consejero

reconoció el retraso en la resolución de estas convocatorias por lo tanto esta convocatoria se resolvió con retraso

en un mes desde la publicación es decir un mes después del diecisiete de octubre ya para noviembre tenían elaborados sus respectivos planes de empleo que presentaron al gobierno vasco el retraso como digo que se resolvió el veinticuatro de abril de dos mil catorce derivó

para el treinta de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de mayo de dos mil quince

ayuda del ejercicio dos mil trece

el gobierno tal y como justifica la nueva resolución ha considerado necesario sacar una nueva convocatoria para el periodo dos mil quince dos mil dieciséis con la misma dotación veinte millónes de euros con cargo a los presupuestos de los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis

un año aproximadamente instando al gobierno vasco a la resolución inmediata de esa convocatoria de dos mil trece ya dijimos que en el año dos mil catorce se corría el riesgo de que fuera un año en blanco en cuanto a la

tenemos esta nueva convocatoria a través de esta nueva resolución del dos mil quince la inacción del gobierno vasco en relación a las convocatorias y a la resolución de estos planes comarcales de empleo

como un año en blanco porque ya anunciamos que se iban a solapar y ya dijimos que era preciso por eso que las convocatorias se resolvieran cuanto antes

la publicación de las sucesivas convocatorias correspondientes a los diferentes años

pudieran presentar en el plazo previsto que así lo hacen sus planes respectivos y luego el gobierno vasco resuelva con agilidad y por lo tanto el dinero pueda llegar a los ayuntamientos desde luego al grupo popular le ha resultado muy llamativo que este gobierno no haya tomado nota

ya reconoció con la resolución de la publicación de la convocatoria

del dos mil trece del diecisiete de octubre del dos mil trece que había habido un retraso por eso nos ha sorprendido

de la convocatoria del año pasado después de ver que el año catorce no ha podido haber una convocatoria pues este año se saque una nueva convocatoria pero

a muy avanzado el ejercicio en su resolución dado que como decía vamos

retraso nosotros planteamos una proposición no de ley con tres aspectos fundamentales que se resuelva a la mayor brevedad posible la resolución de la convocatoria del veinticinco de marzo del dos mil quince los ayuntamientos ya están presentando sus respectivos planes de acuerdo a esta convocatoria y por lo tanto ahora lo que hace falta es que gobierno vasco

y el dinero llegue a los ayuntamientos y también pedimos que se publiquen con antelación suficiente las convocatorias y que su ejecución pueda coincidir con el ejercicio presupuestario con el año natural es que es lo lógico que ustedes puedan sacar la convocatoria como pasó en los años

la convocatoria con la suficiente antelación en el dos mil trece la sacaron el diecisiete de octubre pero qué pasa que luego resolvieron muy tarde

alargar el plazo de ejecución de los proyectos como decía de septiembre de dos mil catorce a mayo de este año porque a los ayuntamientos no les daba tiempo de poner en marcha

en noviembre del dos mil trece por lo tanto hay que intentar

a lanbide hacer los esfuerzos necesarios para que al final

y se pueda resolver de forma que los ayuntamientos estos programas los programas que se vayan a poner en marcha que además van destinados a incentivar el mercado laboral y sobre todo dirigidos a los colectivos

como pueden ser los parados de larga duración por lo tanto nosotros pedimos

ya nos salgamos del juego este del solapamiento de los

se ahorre un dinero porque claro como se van solapando pues el dos mil catorce por ejemplo ha sido un año en blanco y ustedes no han sacado la convocatoria correspondiente y por supuesto como estamos viendo que las dotaciones económicas son de veinte millónes

por ese importe y estos planes en alguna medida son cofinanciados por los ayuntamientos que creemos que ya hacen muchos esfuerzos y que la competencia en materia de empleo

en el gobierno vasco y tiene instrumentos para ello que obviamente se incremente esta cantidad

transacción con el partido socialista que obviamente quiero agradecer su colaboración recogemos un aspecto que ellos contemplaban porque otro aspecto que se refiere a que se ejecuten las convocatorias y se realicen con la antelación suficiente de modo que la ejecución de los proyectos

que nosotros contemplábamos en nuestra iniciativa original digo que la otra cuestión relevante hace referencia a que

los veinte millónes de euros a los que hacía referencia se imputen el cien por ciento al ejercicio presupuestario del dos mil quince y no solo el setenta por ciento al dos mil quince y el treinta por ciento al dos mil dieciséis sino que todo se impute al ejercicio dos mil quince yo creo que les haríamos un enorme favor también a los

la situación económica y viendo que es el gobierno vasco el que puede hacer el esfuerzo yo quiero agradecer también porque espero que esta iniciativa sea también aprobada por otros grupos como es eh bildu y upyd upyd no ha presentado enmienda pero en aras

hemos incorporado otro punto concreto de la enmienda de eh bildu que ya lo incorporamos también el año pasado al acuerdo y creo que es importante hacer hincapié en él que es que estos planes se adecuen a las necesidades y características de cada zona y comarca para hacer frente a los desequilibrios existentes y también que en la contratación

que los programas que se realizan se sujeten a los convenios colectivos vigentes por lo tanto

acuerdo si finalmente es así volvemos a sacarle los colores al gobierno vasco en una cuestión que se repite y esperemos señor toña que no esta usted presente aquí lamentamos que el lehendakari no se haya podido incorporar a esta primera intervención esperamos que lo haga a lo largo del debate pero creemos

enormemente importante y por eso instamos una vez más en esta materia tan prioritaria que el gobierno vasco se ponga

produzca un nuevo perjuicio a los ayuntamientos para la puesta en marcha de los respectivos planes de empleo y que no sean al final los paganos de estos retrasos combatir el desempleo tanto que lo dice este gobierno significa poner en marcha acciones para disminuir el número de desempleados y no dormirse como parece que está haciendo el gobierno vasco a propósito de esta cuestión concreta creemos

consejeros señor lehendakari que no hay razones para el escapismo la autocomplacencia el triunfalismo cuando a pesar obviamente de las buenas noticias de que

por hacer y sobre todo queda mucho por hacer cuando estamos viendo que euskadi crece a un ritmo menor que el resto de comunidades autónomas por lo tanto por favor

para que se resuelvan con la mayor celeridad y los ayuntamientos puedan contar con el dinero que deben de contar para poner en marcha sus respectivos planes de empleo

no sé realmente si las personas más listas están en la bancada del pnv

pero empiezo a temer que sí los más pícaros y si eso es sinónimo de inteligencia habrá que admitir que sí

usted ha hecho una descripción de lo que son los programas planes de empleo local y ha descrito perfectamente cómo

en un auténtico juego de trilerismo los planes de empleo referidos al año dos mil catorce no se han llevado a cabo directamente por lo tanto yo pensaba iniciar esta intervención también hablando de falta de diligencia de que es un exhorto a que se dé más

a que efectivamente y coincidimos en el hecho de que sería por aquello del principio de anualidad muy deseable que esos programas y esos planes coincidancon el año presupuestario

qué programas se están ejecutando coincidimos plenamente señora garrido pero

hasta ahora solo ha habido desoimiento yo voy a ser breve porque prácticamente lo ha dicho todo usted la enmienda que nosotros planteamos y que hace referencia al hecho de que esos veinte millónes se liquiden con cargo al ejercicio dos mil quince

es verdad que la resolución del veinticinco de marzo establece que son catorce millónes al dos mil quince efectivamente coincidiendo con el setenta y el treinta por ciento

claro yo he dicho en alguna ocasión en este pleno y también en comisión quizás de forma excesivamente desdeñosa pero no exenta de realismo

y es que lo vuelvo a destacar aquí el plan que presentó el consejero para el dos mil quince en materia de empleo habla planes de empleo en el ámbito local y comarcal diecinueve millónes es verdad que no son veinte pero se acerca más que los catorce

en ese juego tan crítico y reconozco difícil de seguir difícil de fiscalizar porque es verdaderamente un auténtico

capítulos es verdaderamente difícil y por si fuera una cosa relativa a mis pocas luces lo he contrastado con otros portavoces y veo que tienen dificultades análogas por lo tanto ese principio de anualidad ese ejercicio presupuestario que se corresponda con los planes ya que tuvieron ocasión de esfumar los planes locales de empleo en un ejercicio entendemos que con claridad y con rotundidad este año se tiene que dedicar esa cuantía esa cuantía que además que se anuncia luego en todos estos documentos que aparecen en pantalla y en diapositiva

se puede anunciar planes y programas en sucesivas ocasiones eso nos parece como digo un ejercicio de trilerismo un ejercicio de picardía política que nosotros no podemos aceptar por lo tanto no me extiendo más hemos alcanzado una transacción que lo que le pide al gobierno en los términos que ya se han expresado

a poder ser buscando que coincidan esos planes con el ejercicio presupuestario que se ejecute en este caso el cien por ciento de las cuantías y a poder ser que se dote con mayores cuantías hay algunas quejas también que no voy a plantear aquí pero que en relación a todo esto

estas resoluciones se refieren a ayuntamiento mancomunidades pero

de que tiene que haber delegaciones de los ayuntamientos a las agencias de desarrollo y luego resulta que hay interventores municipales que ponen objeciones a ese tipo

sería interesante que lanbide reconociera abiertamente que las agencias de desarrollo comarcal son entidades con las que se puede dar interlocución directa y puedan ser entidades directamente beneficiarias

de alguna manera intermediar sin que necesariamente sean los ayuntamientos es decir que puede ser una convocatoria indistinta ayuntamientos mancomunidades y agencias de desarrollo

en el dos mil doce en el dos mil doce al que se refiere además esa resolución porque habla que los planes comarcales tienen que estar planteados con arreglo a aquella esto o que si son proyectos de aquel diagnóstico que sean nuevos

digamos la aprobación del pacto que se hizo en aquel momento bueno a las actualizaciones de esos proyectos no ha habido ningún tipo de ayuda es decir cuando las entidades locales quieren

los tiempos además cambian que es una barbaridad si hay que actualizar esos proyectos

lógicamente dotándolos también presupuestariamente y como estas hay algunas otras quejas que sería bueno que se pudieran ventilar pero en fin quizás en otro momento en otro órgano de esta cámara y con mayor detalle en todo caso decir que sí que hemos suscrito esa transacción con total

convicción y decir que entendemos también que euskal herria bildu

de cuestiones estéticas nosotros no nos avergonzamos de suscribir acuerdos con ustedes

la oposición intenta aunque sin conseguirlo demostrar que el gobierno no está tomando las medidas necesarias que el mercado necesita para generar actividad económica y crear empleo pero los datos también son tozudos y ahí están el paro ha disminuido en abril en tres mil novecientos sesenta y cuatro personas la mayor disminución

de los últimos diez años y lo mismo que ustedes se cansan de criticar al gobierno cuando los datos del paro no son buenos

y los efectos de su labor cuando los datos del desempleo mejoran desde el inicio de la legislatura el gobierno tiene marcado como primer eje de su labor el empleo y la reactivación económica para generar las mejores condiciones que faciliten la reactivación económica y la generación de empleo se han ido aprobando diferentes planes con medidas concretas y evaluables aunque a algunos parece que les cuesta poderlo valorar dentro

a las necesidades locales de empleo de cada ámbito territorial y especialmente

en los que los índices de desempleo son más elevados se persigue reforzar la dimensión local de la política de empleo en euskadi definiendo un modelo de intervención flexible

teniendo presente que en euskadi existen zonas donde el desempleo es mayor por lo que la distribución del presupuesto entre las diferentes comarcas y municipios

ahalik eta arinen egingo baitu lanbidek ebazpena lo antes posible pero de forma responsable y siguiendo todos los pasos necesarios de forma que redunde en la creación de empleo de calidad

ezinezkoa da es imposible técnica y jurídicamente realizar la convocatoria resolución y desarrollo en un mismo ejercicio por el propio funcionamiento de la administración primero se ha de aprobar el presupuesto finales de diciembre

de la oficina de control económico y aprobación en el consejo de gobierno para lo cual

dos meses posteriormente se necesita la aprobación en el consejo de administración de lanbide un mes más para la presentación de proyectos un período de hasta seis meses para la resolución de los mismos por parte de lanbide dependiendo de la entidad de los proyectos

siendo la duración de la mayoría de seis meses e intentando impulsar los contratos más largos las acciones efectuadas al amparo de la ayuda se han de justificar por parte de los contratantes en el plazo de tres meses

de los contratos el pago se realiza entre uno y dos meses a contar desde el plazo anterior todo el proceso dura dieciocho meses como mínimo por lo tanto lo que solicita el partido popular en su punto segundo y el partido socialista en el primero y que se ha recogido en la transaccional al sol imposible de cumplir material y jurídicamente es como si pidiéramos al gobierno que haga coincidir un curso escolar con un único ejercicio por lo tanto no apoyaremos esta petición de imposible cumplimiento

es pronto para hablar de presupuestos a nuestro juicio señora garrido ya tendremos tiempo

el anteproyecto y también el partido socialista ahí tendrá algo que decir supongo alderdi sozialistaren zuzenketari dagokionez lehenengo puntua ezin dugu

epeetan banatu zituen ordainketak eta ez zuen bat ere ez ordaindu por lo tanto señor itxaso consejos vendo que para mí no los tengo

cuando los entes locales contratan directamente en este caso decirle que eudel se ha manifestado a favor de aplicar las condiciones udalhitz que en muchos casos

están muy por encima de los convenios en vigor por otro lado cuando son las empresas privadas las contratantes que las condiciones de contratación a aplicar son las de su ámbito

maneiro jauna mistoa zurea da hitza presidenta únicamente para decir que votaré a favor de la transaccional que ha sido firmada gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidenta agradecer a los grupos que van a apoyar esta iniciativa que

de la oposición excepto el partido que apoya el gobierno decía la señora

porque vemos nuevamente que esto se repite esto ya lo denunciamos el año pasado presentamos iniciativas concretas por cierto no a propósito solo de esta cuestión

comarcales de empleo también tuvimos que presentar otra iniciativa en relación a los planes que tienen que ver con el emprendimiento porque ustedes no resolvían las convocatorias y el dinero no llegaba

refiriendo de emprendimiento personas que habían contado con un dinero para poner en marchas sus negocios estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de cuestiones que son absolutamente prioritarias

es algo prioritario como son las cuestiones relacionadas con el empleo y el impulso del empleo cuando vemos que luego los hechos no le acompañan cuando luego llega el momento de la verdad y tenemos que ver cómo una convocatoria del dos mil trece que sale con tiempo suficiente que los ayuntamientos presentan sus planes respectivos con un mes

y a raíz de que se presenta una iniciativa en este parlamento en este caso por este grupo pero que fue apoyada por el resto de los grupos con representación en esta cámara de la oposición

aprobaron la resolución que resolvía estas convocatorias y que posibilitaba que el dinero llegara a los ayuntamientos pero fue con unos cuantos meses de retraso como lo reconoció el señor aburto

a que tuvieran que prologar el plazo de ejecución de los programas que estaba previsto para el treinta de septiembre del dos mil catorce a treinta y uno de mayo de este año es decir ya el año pasado hubo que

no daba tiempo a poner en marcha esos programas con ese dinero habilitado como digo

en octubre pero es que luego el dos mil catorce se lo saltan el dos mil catorce para qué y la convocatoria respecto a este año lo han sacado ahora

y así vamos con el año natural y vamos con la ejecución del correspondiente año presupuestario que sería lo correcto y que era la intención inicial de este gobierno cuando

no fue la primera pero saca la convocatoria el diecisiete de octubre del dos mil trece por lo tanto

y lo que queda claro una vez más en relación a este asunto y que es una muestra muy significativa de la actuación de este gobierno en relación al empleo que se le llena la boca de que es algo prioritario pero cuando llegan los hechos concretos y las actuaciones no las convierte en prioritarias porque sino ustedes sacarían las convocatorias con antelación estamos hablando de veinte millónes de euros

para que los ayuntamientos puedan poner en marcha proyectos concretos programas concretos que se destinan a las personas además

de inserción en el mercado laboral es decir no estamos hablando de un programa

yo creo que ustedes está claro que cuando llega el momento de la verdad no muestra un compromiso sincero

que esto es una acción y uno de los ejes estratégicos de este gobierno y por lo tanto yo les pediría que dejen de engañar a la ciudadanía que se pongan manos a la obra porque desde luego los ciudadanos vascos creo y sobre todo aquellas personas que están en

sí señora arregi le voy a felicitar por la reducción del paro

que puede simultanear no llegan a las cuarenta horas en esa senda podremos encontrarnos con que haya en el futuro más empleos que población activa efectivamente

nosotros nunca se las vamos a imputar como una responsabilidad al gobierno podremos tener en cuenta

cómo se está comportando el mercado de trabajo y cómo se está planteando

de los resultados de las políticas o no sino de los compromisos de los compromisos que el gobierno tiene entonces dice bueno es que estos procedimientos duran dieciocho meses bueno el año tiene dieciocho meses

no pretendan que sobre la base de un procedimiento cuyo tiempo de maduración se extiende más allá de año hacer esfumarse un ejercicio el del dos mil catorce el del dos mil catorce respóndame si esa convocatoria correspondiente al dos mil catorce no ha existido a dónde va a parar el dinero con que habría que haber dotado un plan en ese ejercicio

precisamente por el tiempo en el que madura estos procedimientos hay que imputar a un ejercicio y al siguiente

a dónde va a parar el dinero o el diferencial que hay entre los catorce millónes que dice la resolución de veinticinco de marzo que se imputan al dos mil quince y los diecinueve que aparecen en este documento del gobierno a dónde van a parar a economías también

nos parece serio y grave no esperamos que esas políticas activas de empleo vayan a dar por si mismo

pero la obligación de los gobiernos y de los poderes públicos es llevarlas a cabo de la manera más eficiente posible y no sustraerse a esas obligaciones en base a estas cuestiones de que bueno es que en fin es que esto dura más tiempo es que hay que imputarlo es que al final por eso he dicho en la primera intervención que hay un ejercicio de trilerismo notable porque al final en este periodo un ejercicio

no aparece por ningún lado y como digo y aquí que se anuncia diecinueve millónes de euros para los planes locales de empleo resulta que en esa resolución habla del setenta por ciento de veinte que son catorce y por lo tanto con respecto a este powerpoint hay un diferencial de cinco millónes

con las políticas activas de empleo todos los recursos disponibles a ellas y en el ejercicio que corresponda eskerrik asko itxaso jauna

dos tres cuestiones a la señora arregi con respecto al primer punto de nuestra enmienda en el que bueno solicitamos que estos planes se tienen que hacer

o teniendo en cuenta las necesidades reales de cada comarca y en el que para hacer esos diferentes planes comarcales tienen que participar los diferentes agentes

en esos planes que puedan hacer propuestas eficientes me ha comentado que ya se está haciendo le digo que no es así sabemos que en algunas comarcas

muchos agentes están participando de forma muy activa pero en otras no es así

es una realidad incuestionable y con respecto al segundo punto sí que en mi primera intervención he intentado aclarar que sabemos que sobre todo esas

dando condiciones sobre todo salariales precarias son en las de la linea dos en las contrataciones a las empresas sabemos que o por lo menos las que más conocemos se han dado en esa línea y por eso decíamos lo del tema de los convenios

si en los ayuntamientos ha ocurrido algo de esto evidentemente

aclarar que tratamos de que se aplique el convenio de referencia bien sectorial o bien en su caso si hubiera

o de empresa que mejore las condiciones lo voy a leer textualmente no obstante en el caso de que en el centro que se presta a sus funciones exista un convenio o pacto

sin perjuicio de que sea renovado siempre y cuando sus condiciones sean superiores a las recogidas en el convenio del sector evidentemente si el udalhitz mejora

se aplique el udalhitz y décimos con respecto a la primera parte de este punto de que se aplique el último

reforma laboral muchos convenios han decaído hay miles de trabajadores

y hay muchas empresas que están aplicando las condiciones mínimas que establece el estatuto del trabajador eso es legal

es legal pues evidentemente sí creemos que con dinero público y con los programas que desarrolla el gobierno vasco se tienen que subvencionar este tipo de contrataciones

berriz ere legebiltzarburu andrea el gobierno vasco apuesta por las ayudas para acciones locales de promoción de empleo y su compromiso es firme

una vez más la oposición en vez de reconocer los pasos dados

la labor del gobierno y lo que es más grave a nuestro juicio con absoluta irresponsabilidad acuerda instar al gobierno a cumplir algo en un plazo

jurídica y materialmente e insisto con el ejemplo que he dado en mi primera intervención porque es muy clarificador es como pedirle al gobierno que el curso escolar coincida con un único ejercicio he numerado los trámites y los plazos necesarios al respecto qué plazos creen que se pueden acordar u omitir

los de subsanación de errores los de verificación de la documentación pues a nuestro entender ninguno puede ni debe ser recortado porque de hacerlo perjudicaría al resultado buscado por estas ayudas afectaría a la calidad de la que tantas

nosotros no estamos dispuestos a que la calidad de los contratos se vea afectada por reducir los plazos su actitud es

no se puede instar al cumplimiento de los plazos que no es posible llevar a cabo además el plazo dado para la revisión de la documentación es una forma de control del dinero público otra exigencia que se hace una y otra vez y que nosotros evidentemente que compartimos pero compartimos en todos los casos y para poder hacer ese control hace falta tiempo y plazos

la convocatoria del dos mil catorce la única convocatoria que no ha existido es la del año dos mil doce que se publicó en agosto del dos mil doce con tres plazos para pagar

tres plazos cuarenta por ciento tras la resolución de lanbide se decía treinta y cinco por ciento

y validación pero no se hizo porque ustedes se marcharon del gobierno y lo dejaron sin resolver y sin abonar ni una sola de las cantidades

etcétera se cree el ladrón que todos son de su condición pero ese y así no actuamos señor itxaso y por último a la señora

decirle que claro que lanbide está y usted en su primera intervención ha hablado que de estas ayudas una de las líneas es para favorecer aquellas comarcas
que están degradadas y en las cuales la situación de desempleo es peor isiltasuna
por lo tanto está haciendo eso lanbide a pesar de que usted ahora en la segunda

lo haya negado lanbide sí que fomenta y ayuda a esas comarcas que están

presidenta el pasado día uno de abril el lehendakari compareció

para realizar un balance del programa hitzeman y para anunciar que la primera experiencia para ayudar a la reinserción de presos de eta

y todo ello a pesar de que el gobierno vasco carece de competencia en materia de política penitenciaria el objetivo de esta iniciativa parlamentaria es impedir que se produzca ningún tipo de impunidad de la que se puedan beneficiar los presos de eta
isiltasuna mesedez y que se cumpla estrictamente

incluidos todos los requisitos que la ley establece para que los presos de eta puedan acceder a beneficios penitenciarios cosa que el gobierno vasco y determinados partidos políticos

y no olvidamos ni uno solo de los requisitos perfectamente establecidos en la ley para que los presos de eta puedan acceder a beneficios penitenciarios por lo tanto con nuestra propuesta

lo siguiente tres puntos el primero de ellos que este parlamento recuerde al gobierno vasco que la competencia en política penitenciaria corresponde al gobierno de españa el segundo punto que este parlamento rechace el programa hitzeman del gobierno vasco así como el propio plan de paz y convivencia donde aquel programa se incluye

en la convivencia en euskadi la justicia que las víctimas del terrorismo merecen y la derrota definitiva de eta finalmente proponíamos instar al gobierno de españa a que en el desarrollo y aplicación de la política penitenciaria

y para impedir cualquier tipo de impunidad o injusticia aplique rigurosa y estrictamente el código penal la ley general penitenciaria y el reglamento penitenciario de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento

de todos los requisitos legalmente establecidos y sin ningún tipo de excepción es decir desvinculación definitiva de la banda terrorista petición de perdón a sus víctimas asunción de la responsabilidad civil derivada

por las que fue condenado y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la justicia que permita resolver o ayudar a resolver

de resolución especialmente importante es este último requisito

incumplido el cumplimiento riguroso de este requisito ayudaría a resolver los más de trescientos crímenes cometidos por eta pendientes de resolución

arrepentido y por tanto en disposición de reinsertarse en la sociedad está perfectamente comprobado

de beneficios penitenciarios no han colaborado porque no han querido con la justicia y sin embargo han podido disfrutar de esos beneficios por lo tanto se ha incumplido la ley se ha producido un fraude de ley

defendemos esta iniciativa para defender a las víctimas del terrorismo y la justicia que implica el cumplimiento estricto de la legalidad vigente sin trampas

y estrictamente cosa que ya digo que ayudaría a esclarecer los crímenes cometidos por eta pendientes de resolución repasemos rápidamente la legalidad vigente el mayor beneficio penitenciario contemplado en la ley es la libertad condicional

los requisitos para acceder a la libertad condicional son estar clasificado en tercer grado penitenciario

y haber mostrado buena conducta y un pronostico favorable de reinserción

según el código penal se entenderá que hay pronostico favorable de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades

captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas si se niegan a colaborar con la justicia es que no están reinsertados ni quieren reinsertarse y además incumplirían uno de los requisitos para acceder a esos beneficios penitenciarios el paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado

el artículo setenta y dos punto seis de la ley general penitenciaria es también claro la clasificación o progresión al tercer grado de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales requerirá además de los requisitos previstos por el código penal

con sus rentas y patrimonio presentes y futuros que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además hayan colaborado

con las autoridades por lo tanto la ley es clara y este gobierno vasco lo que pretende es o bien saltarse la legalidad vigente o bien cambiarla y nosotros creemos que la ley está bien como está y que en todo caso lo que debe hacerse es con mayor rigor el programa hitzeman fue presentado en octubre de dos mil catorce una hoja de ruta según se decía que busca profundizar en la vía legal y constitucional de resocialización de las personas presas

de prisión exige una reflexión autocrítica del daño injusto causado y según el lehendakari viene a cubrir las lagunas y el inmovilismo que el gobierno vasco ve en la política de estado en relación a los presos de eta se trata de un programa de apoyo a los procesos legales de resocialización

este plan piloto que nosotros rechazamos tiene además al menos dos dificultades evidentes las competencias en materia penitenciaria son del gobierno de españa pero es que además el gobierno vasco aún no ha logrado el compromiso de ningún recluso para sumarse a hitzeman según jonan fernández ha habido una fase de consultas ha tenido buena acogida pero como no ha habido una fase de inscripción

inscritas y en este punto habría que recordar que el gobierno cuando presentó este programa se dio un plazo de cinco meses para consensuarlo con el resto de partidos políticos en este asunto como en tantos otros tampoco ha habido ningún tipo de diálogo ni ningún tipo por lo tanto no solo no lo ha consensuado como prometió sino que además ha sido un fracaso solo ha servido para deslegitimar la legalidad vigente para poner en cuestión la legalidad vigente

el señor jonan fernández hablaba de explorar el potencial

ofrece cuando presentó este programa nosotros pensamosque más que explorar el potencial que la legalidad ofrece lo que hay que hacer es cumplirla

recogen veinte medidas relacionadas con la política penitenciaria que se aplica a los presos de eta

el estado de normalidad en el derecho penal y penitenciario y contribuir a la normalización social y política de la convivencia rechazamos este programa un programa que incluye diez propuestas de cambio en la política penitenciaria sin modificación legal y otras diez propuestas modificación legal rechazamos lo fundamental de lo que se propone en ese programa qué es lo que se propone en ese programa entre otras medidas

suprimir el delito de apología del terrorismo liberar a los condenados por actividades se dice antes ilegalizadas y ahora normalizadas es decir

de algunos presos la derogación de la ley orgánica siete barra dos mil tres de medidas de cumplimiento íntegro de las penas

determinados requisitos para acceder a beneficios penitenciarios entre otras nosotros rechazamos también todos estos propósitos todos ellos favorables a los presos de eta en la misma comparecencia el lehendakari

una medida adicional a las dieciocho iniciativas del plan de paz y convivencia del gobierno vasco un documento según se dice para propiciar

ante la parálisis en que se encuentra se decía el proceso de del terrorismo otra vez un programa otra vez un plan para favorecer

rechazamos contundentemente y por lo tanto con esta iniciativa lo que proponíamos es que este parlamento pida al gobierno que retire todo ello el actual plan de paz y convivencia el programa zuzenbidean el programa hitzeman y el plan

que retire todo eso y busque el consenso con los partidos políticos democráticos para centrarse

la defensa de la legalidad vigente la exigencia a eta para que se disuelva cuanto antes y entregue las armas la deslegitimación del terrorismo

la defensa de estas víctimas del terrorismo y que y seguramente sea lo más importante que este gobierno busque el consenso que busque el acuerdo con los grupos políticos parlamentarios de este parlamento con aquellos grupo políticos democráticos esto es lo que debería hacer en este asunto el gobierno vasco

para saltarse la legalidad vigente y otra cosa muy distinta es que los partidos políticos democráticos vayamos a permitírselo una cosa es que el gobierno vasco del pnv

y otra que los partidos democráticos vayamos a permanecer

los propósitos de este gobierno vasco que en infinidad de cuestiones está más cercano

que a las víctimas del terrorismo por lo tanto lo que habría que hacer seria según la transaccional que hemos firmado es reformular

evitar cualquier tipo de impunidad deslegitimar a eta defender a las víctimas del terrorismo y buscar el acuerdo con los partidos políticos democráticos

y con el grupo socialista en la que se recoge lo que nosotros consideramos más importante constatar el fracaso del plan de paz y convivencia instar al gobierno a que reformule su plan de paz y convivencia en base

y finalmente instar al gobierno de españa a que impulse una política penitenciaria que facilite la reinserción pero que se haga a través de los mecanismos establecidos en le ley que se cumpla la legalidad vigente incluimos la exigencia al gobierno de españa para que haga cumplir todos los requisitos establecidos en la legalidad vigente para que los presos de eta puedan acceder

la ley en definitiva que se defienda la justicia que no pueda haber ningún tipo de impunidad pedimos por tanto que el gobierno vasco en lo importante que abandone sus propuestas que solo pretenden contentar

que dialogue y busque el acuerdo con los partidos políticos democráticos que exija a eta definitiva e incondicional que exija a los presos que acepten la legalidad vigente y que defienda en última instancia a las víctimas y obviamente que deslegitime

defendemos en esta iniciativa y en la transaccional que finalmente hemos firmado únicamente me queda agradecer

la firma de esta transaccional que creo que recoge lo fundamental

gracias señora presidenta comenzaré lamentando la ausencia del gobierno es incomprensible que en un debate en el que estamos discutiendo

uno de los ejes de la acción del gobierno

por mucho que se predique diálogo ni siquiera se escucha a los grupos de la oposición

del gobierno que sinceramente los socialistas lamentamos en muchas ocasiones señorías hemos dicho y hoy lo reitero que los socialistas

oposición con estas cuestiones al gobierno otra cosa es que por iniciativa del gobierno

tengamos que pronunciarnos y lo haremos lo haremos con claridad y con contundencia para que nadie interprete ni confunda responsabilidad y prudencia con asentimiento o respaldo a políticas y planes que no compartimos nosotros seguimos pensando que la mejor política de memoria convivencia y víctimas es aquella que se hace desde el máximo consenso la que se sustenta sobre principios éticos y democráticos básicos y hoy

convivencia y víctimas tenemos que decir que hay menos consensos que ayer la desconfianza y el alejamiento de las víctimas del terrorismo hacia el gobierno es un hecho la relación institucional y el diálogo con el gobierno central es nula

de los presos condenados por terrorismo se ha abandonado y el gobierno

un plan que reforzara y desarrollara los acuerdos que tanto costó tejer en la legislatura pasada sobre memoria convivencia y víctimas ha optado por lo contrario ha optado por aprobar un plan sin aceptar ninguna sugerencia de fondo

ha optado por un plan en el que no tenga acuerdo insisto ni con el gobierno de españa ni con las víctimas un plan mal enfocado confuso

simplemente citaré algunos ejemplos un plan que habla de muertes en vez de hablar de asesinatos que habla de personas presas en vez de hablar de presos del terrorismo un plan que rebaja claramente las exigencias a eta

un plan que equipara víctimas en fin un quiero y no puedo lleno de iniciativas pero que son brindis al sol

de encargar cuantiosos estudios e informes con costes importantes para las arcas públicas y todo ello como ya hemos dicho en otras ocasiones

que les llevara a poder pactar con el gobierno fue un mal comienzo la elaboración de este plan y los sucesivos planes que los desarrollan auguraban su fracaso como así ha sido

por mucho que el gobierno se empeñe y se empeña mucho en hacer balances positivos

un breve análisis del plan demuestra claramente su fracaso se lo dije el otro día al lehendakari veamos el plan tenía como objetivo prioritario conseguir el desarme de eta y que esta desapareciera definitivamente ha servido

ha conseguido algún objetivo no el segundo gran objetivo del plan era conseguir lo que el gobierno llamaba micro acuerdos

se ha conseguido alguno no y no es posible conseguirlos

no estamos dispuestos a rebajar principios éticos y democráticos básicos el suelo ético para conseguir esos acuerdos y tampoco se pueden conseguir acuerdos que contribuyan a la desmemoria ni a facilitar que se diluyan responsabilidades de quienes apoyaron durante tantos años

señorías después de un año de enredos del gobierno con eh bildu se está demostrando que eh bildu no está en predisposición de reconocer el daño causado

y por supuesto no están dispuestos a asumir que matar apoyar al terrorismo

una vez más se demuestra lo que ya estaba demostrado en el pasado que eh bildu

que eta que los presos de eta solo se mueven desde la exigencia y desde la firmeza tampoco

más allá de que el texto rebajaba exigencias a los presos y en todo caso como ya dijimos en su momento nosotros no compartimos el programa

daba lugar a situaciones de confusión que no se pueden aceptar no era exigente con el mundo de eta y su entorno no era adecuado hablar de resocialización en vez de hablar de reinserción por mucho que se quisiera facilitar con términos suaves

también dijimos que no nos gustaba ni siquiera su nombre porque en castellano

pueden decidir si quieren su futuro con claridad el problema es que no lo hacen y por supuesto ya dijimos que eran iniciativas de voluntarismo porque

un brindis al sol y también dijimos en su momento que los presos de eta sus familiares su entorno político

en las exigencias y se confirmó con claridad el portavoz de

que era un brindis al sol también en esto fracaso de las políticas del gobierno también hoy hay menos consenso en política de memoria que había en la legislatura pasada y por supuesto también fracaso clamoroso

en sus políticas referidas a otras víctimas aquellas que no están amparadas en la ley de víctimas del terrorismo porque se han empeñado en hacer un decreto

y que después ha sido claramente rechazado por la justicia en fin y en resumen uno de los ejes fundamentales de la política del gobierno ha sido un clamoroso fracaso y por eso los socialistas

una enmienda para no perder el tiempo para intentar que el gobierno entienda que tiene que hacer autocrítica y reformular el plan de convivencia su plan de paz y convivencia una enmienda que como ya ha dicho el señor maneiro se ha convertido

y con el pp que aprovecho para dar las gracias también por su generosidad y disposición al diálogo que tiene como objetivos

primero que le pedimos al gobierno que reformule el plan

un plan que tenga como objetivo no el desarme de eta sino su desaparición incondicional y que así se diga con toda claridad en el contenido del mismo

con claridad y con veracidad lo ocurrido en este país durante tantos años de terrorismo también un plan que siga impulsando el reconocimiento y la atención a las víctimas y por supuesto que con rigor histórico con rigor profesional ajustado a la ley también se sigue atendiendo a las llamadas otras víctimas

y que ayude a la reinserción social de los presos que cumplan los requisitos que están establecidos en nuestra legislación un plan que apueste por consolidar la convivencia perosustentada en valores éticos y democrático sólidos y compartidos que deje claro que la violencia nunca tuvo

justificación señorías como pueden comprobar

paz y libertad es lo que ya hemos conquistado y lo que disfrutamos hoy por eso

de memoria víctimas y convivencia para que aprovechemos lo que queda de legislatura para que no sea una legislatura perdida en estas materias pedimos

que reconozca el fracaso de sus propuestas y de su plan que reformule el plan de convivencia sobre los ejes que he dicho que es lo que nos permitirá asentar la convivencia

que construya su futuro respetando las reglas de juego y respetando

señoras y señores parlamentarios buenos días bueno yo no me extenderé mucho el señor maneiro y el señor ares han explicado esencialmente

de la misma yo tendría que decir que la secretaría de paz y convivencia no está haciendo las cosas bien y por ello y en ese sentido compartimos los planteamientos que ha realizado el proponente de la iniciativa y luego los que hemos reflejado en la transacción

para unir es un plan hecho para dar satisfacción progresiva al mundo radical esa es la clave del plan ya lo hemos dicho en comisión al señor fernández y también en pleno de control al propio señor

y convivencia el gobierno vasco y especialmente el señor fernández se están el pañuelo naranja lamentablemente el programa hitzeman y el resto de actuaciones ya lo han explicado

nunca puede ser útil bajo las premisas de actuación del gobierno vasco y de su secretaría este programa se mueve al margen del sistema legal y del respeto competencial y eso es una cuestión clave en cuestiones tan complejas y tan delicadas como esta hace poco más de dos años

ámbitos que el propio urkullu quería controlar desde presidencia

qué cerca están esos dos años pero qué cantidad de tiempo

retroceso democrático para tanta cesión ante la radicalidad y para tanta distorsión dos de las últimas expresiones del retroceso han estado

encarcelado y también con la asociación de familiares de eta a la que tuvo a bien unirse el presidente del gobierno vasco son dos ejemplos pero que definen un poco el marco de actuación de la secretaría y del gobierno

sustentada en la equidistancia moral en el

y en la crítica al gobierno central un retroceso de los dos años largos de actividad de una secretaría que para lo que ha servido es para dar la espalda a las víctimas y para rebajar la exigencia de los demócratas hacia el mundo de bildu y de sortu sin embargo en el marco de actuaciones ha servido desde el minuto uno equiparar y mezclar violencias ha sido imposible que el gobierno vasco haya analizado y aislado la violencia de eta y el terrorismo se ha tratado de seguir consagrando la teoría del conflicto por activa y por pasiva se trata de concluir con que euskadi ha sido una sociedad enfrentada y que eta es una parte de ese conflicto y esa mentira es

de bueno una obsesión enfermiza por confrontar con el gobierno central es decir

de una crítica proforma hacia el mundo de eta y la izquierda hay una diatriba a veces brutal contra la política penitenciaria de españa contra la actuación de la justicia de los cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra la organización terrorista aún no disuelta

no existe actuación específica en el plan fernández y en sus desarrollos por construir un discurso deslegitimador de eta y a renglón seguido

de los grupos no nacionalistas y las exigencias básicas eso es buscar el acuerdo eso es buscar el consenso la ponencia

pnv bildu más que expresa y real

lo que se opina en el marco de esta actuación de la constitución del estatuto e incluso algunos consensos básicos como la ley de amnistía

se ponen en entredicho en estas claves están además las celebraciones las conmemoraciones el gobierno vasco hace un totum revolutum de violencias

abstractas que diluyen la cara y ojos de quienes más han sufrido en euskadi en los últimos años de la brutalidad etarra como recordó un asesor del lehendakari

al gobierno de urkullu le falta hacer un gesto con las víctimas y eso fue hace ya más de un año seguimos esperando el señor fernández no ha dado

condenen el terrorismo de eta sus crímenes y exijan su disolución no lo ha dado

y sin embargo exige a los demás microacuerdos para seguir cediendo ante los violentos

absolutamente incapaz se ha demostrado el señor secretario de paz y convivencia

un ámbito de incomodidad pública para la izquierda abertzale

hemos firmado una enmienda de transacción con el proponente y con el grupo socialista a los que agradecemos la disposición yo creo que hay que analizar ese acuerdo es una exigencia

pero en cualquier caso yo creo que aquí hay una crítica contundente y tremenda a la actuación

de paz y convivencia en relación con esa búsqueda de acuerdos

es clara ya la han explicado tanto el señor maneiro como el señor ares en relación con constatar ese fracaso

que éramos llamados a participar a buscar acuerdos o consensos en relación con esas materias pero desde

o posibilidad se insta al gobierno en esta enmienda a una serie de cuestiones que quedan pendientes como bien

lo que se pide es que se cumpla la ley nosotros entendemos que eso se está haciendo por parte del gobierno de españa pero en cualquier caso si hablamos de resocialización y de reinserción de los presos está bien claro que hay que cumplir la ley en todos sus

maneiro hay que alejarse de la violencia hay que reconocer el daño causado y hay que cumplir todos los requisitos que marca la ley en relación

ez dadin indarra egiteko consideramos que la iniciativa que hoy trae upyd es única y exclusivamente para marcar terreno para mostrarse el más irresponsable el más vengativo el más opuesto a dar pasos en positivo sabedor de que

vendrá después el pp y el partido socialista

quedarse atrás nuevamente se hace apología de la imposición de la coacción a presos y a su círculo social no sé

o tal y como hoy está siendo ya un argumento recurrente porque esa es su tarjeta de presentación electoral sea un motivo o el otro el hecho es que se trae esta iniciativa única y exclusivamente para recordarnos cuáles son esos requisitos de la ley siete barra dos mil tres para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas

una ley que se asienta en la humillación una ley que se asienta en el arrepentimiento del preso banderas que hoy nuevamente upyd pp

ondean prepotentes en esa enmienda transaccional una ley especial

que solo puede entenderse en su contexto en aquel contexto del dos mil tres cuando se redactó en el apogeo de la era aznar en plena borrachera

aquella estrategia global y sostenida de vulneración generalizada de derechos civiles de derechos políticos de derechos procesales

se empeñan en mantener firme en su rumbo porque no tienen otro proyecto para este pueblo porque no tienen otra receta que merezca llamarse de normalización política o de convivencia esta política excepcional que se aplica a los presos vascos supone

del estado de derecho para dar paso al derecho del estado el derecho que el estado improvisa ante sus prioridades ante sus intereses

que pasa de la fuerza de la razón a la razón de la fuerza con la que el estado no hace sino dotarse de más herramientas de más discrecionalidad

una obsesión que ha arramblado deliberadamente con infinidad de derechos en este caso de un destinatario concreto el colectivo de presos políticos vascos

el de legalidad o de seguridad jurídica el de acceso o ejercicio de la libertad personal son ahora tras esta ley papel mojado cierto legal pero igualmente ilegítima

privada y familiar su derecho a la integridad física a la atención médica a la comunicación al estudio su derecho al acceso a la libertad de ese acerbo de arbitrariedad se quiere vanagloriar hoy

y por eso precisamente decaerá su iniciativa ez bake edo bizikidetzarako planarekin ados gaudelako

no hemos presentado enmienda porque no estamos dispuestos a seguir haciendo el juego al señor maneiro que es muy tiene toda la legitimidad del mundo para presentar las iniciativas que considere oportunas pero son que responden a su estrategia política a sus obsesiones políticas la mayoría de ellas basadas sobre afirmaciones falsas sobre acusaciones falsas sobre prejuicios

de las victimarios que de las víctimas etcétera etcétera y como son

resisten el más mínimo contraste el más mínimo análisis pues no vamos a perder el tiempo

nuestra postura está clara está basada en los acuerdos de la ponencia

anterior y sobre ese edificio está edificado el plan de convivencia de paz y convivencia del gobierno vasco por lo tanto no vamos a votar la retirada del plan por responsabilidad

por compromiso con la sociedad vasca con los agentes con las entidades que trabajan

por el grado de cumplimiento del plan porque avanza progresa adecuadamente las dieciocho iniciativas comprometidas están en marcha con un grado satisfactorio de cumplimiento salvo por cierto el centro memorial de víctimas del terrorismo que corresponde al gobierno central y creo que poco más deberíamos incidir en esto

evidentemente no vamos a ya he dicho que no vamos a votar la retirada del plan y respecto al cumplimiento de la legalidad evidentemente es lo que el plan

documentos de desarrollo del mismo hitzeman zuzenbidean

se basan en el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y sobre esa base establecen las propuestas activas las políticas activas para desbloquear una situación que se hace insostenible inaguantable para la mayoría de la sociedad salvo para

y que estamos dando la espalda a lo que la sociedad demanda de nosotros el gobierno vasco no no se ha puesto ningún pañuelo ni naranja ni de ningún otro jalón color señor barrio aquí el único que se ha puesto no un pañuelo una venda en los ojos y unas cuerdas en las manos

en este tema es el partido popular y el gobierno del señor rajoy que está absolutamente enrocado en una posición

y que no responde a ninguna de las llamadas especialmente dolorosa es la enmienda del partido socialista

no tanto por la enmienda sino por el discurso del señor ares en esta tribuna

por ser suave una solemne contradicción piden reformular el plan

reformulación como retirada del plan o como evaluación continua del mismo porque se trata de eso

y semestralmente y no solamente se evalúa el plan se presenta la evaluación

no solamente del parlamento sino de toda la sociedad para su contraste sino además porque en la segunda parte pide que se reformule sobre cinco ejes que la verdad es que cuando vi la enmienda me quede absolutamente sorprendido porque sobre cinco ejes que son exactamente los ejes

sobre esos ejes más allá de pequeñas anécdotas que pretendo justificar un cambio de posición del partido socialista en todo esto

porque se utiliza resocialización en vez de reinserción estamos de acuerdo o no con el diagnóstico del plan de paz y convivencia que está basado y lo dice expresamente que hace suyo

el suelo ético pactado por el parlamento vasco acordado por el parlamento en la anterior legislatura pero los cinco ejes a los que hace referencia el partido socialista

el primer objetivo explicito el plan desaparición o disolución los dos términos la política memoria del plan de paz busca la inclusión y se basa en la clasificación de la verdad como

justicia y reparación hacia todas las víctimas oponiéndose expresamente expresamente en el plan a cualquier juego de compensación y no solo en el plan

se hace referencia a no entrar en juegos de compensación o de justificación de ninguna de las violencias

habla usted de favorecer los procesos legales de reinserción de presos el programa hitzeman es precisamente eso para eso que usted pide en ese cuarto eje y la política de convivencia del gobierno vasco y del plan de paz y convivencia se basa en una memoria crítica del terrorismo y de la violencia y de la injusticia cometida contra las víctimas

o legitimación del uso de la violencia es pura pura suelo ético es puras conclusiones de la ponencia del parlamento anterior

efectivamente no están los tiempos no son favorables al consenso parece ser por cierto habla usted también en esa lista de fracasos que

lo dice quien tiene la incoherencia de firmar una enmienda de totalidad con el partido popular que habla de la memoria con el mismo partido popular que vota en contra de su propuesta fundamental en esta legislatura en materia de memoria que es la ley de creación del instituto de la memoria y la convivencia me quiere

a la que defiende el señor barrio a la que defiende el partido popular en el desarrollo en los debates

o la que defiende usted y defendíamos nosotros en el proyecto de ley y en la ley aprobada evidentemente hay que buscar consensos

y desgraciadamente es verdad aquí todos ustedes desde eh bildu hasta upyd han dicho que no están de acuerdo

pero es que desgraciadamente lo justifican exactamente por lo contrario unos

que da por buena una legislación de excepción y que

a los presos de eta y los demás por exactamente lo contrario por tratarse de un plan que solamente está mirando a los presos en facilitar el camino a los presos en quitar exigencias a los presos

argumentos utilizados son ciertos ninguno de los dos responden a la verdad pues no hay ningún proyecto ningún proyecto en esta cámara que tenga un consenso mayor porque conseguir un consenso para decir estoy en contra de eso es lo más sencillo del mundo pero y el siguiente paso sobre qué en torno a qué estamos por

en torno a los acuerdos aprobados y firmados por este partido en todos estos años con ustedes que se materializan en las conclusiones de la ponencia de paz y convivencia de la legislatura anterior y en esta legislatura básicamente en el desarrollo legislativo del instituto a la memoria pero dos consensua si uno quiere y es muy difícil consensuar

al instrumento parlamentario creado para dialogar y es imposible acordar si no hay diálogo previo y el problema no es que ustedes se nieguen a acordar con eh bildu que acuerdan muchas cosas el problema es que ustedes a dialogar con cualquiera porque no se sientan en la mesa esa es

sí gracias presidenta menos mal señor iturrate que no iba a intervenir o que iba a intervenir brevemente y que no pretendía hacer

más allá desde luego yo aquí no he venido a hacer ningún juego

y no he venido a defender los mismo mantras que siempre he venido a defender los principios que upyd llevan defendiendo durante los últimos años y por cierto hemos logrado acordar

con el grupo popular y el grupo socialista y eso ya es algo ya es bastante más allá de que nos diferencien determinadas cuestiones tal como se ha visto en los últimos meses en este parlamento y en concreto en relación a esta cuestión

de acordar una transaccional y lo que se evidencia otra vez es que el partido nacionalista vasco es incapaz de dialogar y de acordar nada con ningún otro grupo parlamentario y da la sensación de que efectivamente ustedes están ciegos

no se dan cuenta que hay una mayoría en este parlamento que le está diciendo que no está de acuerdo con estas iniciativas que ustedes están impulsando y en todo caso

lo que creo que ustedes deberían hacer es acercarse a los partidos políticos democráticos de esta cámara

que durante largos años han sufrido las acciones terroristas de eta pero ustedes son incapaces de ceder absolutamente nada y siguen ciegos y sordos los tres grupos estamos diciendo de manera contundente que estamos en contra del actual plan y convivencia que estamos en contra del programa hitzeman que estamos en contra del programa zuzenbidean y que estamos en contra del plan

los grupos políticos democráticos con los que ustedes deberían intentar al menos acordar en una cuestión tan sensible como esta pero en fin

lo cierto es que prefieren seguir en su más absoluta soledad

se puede evidenciar por un lado que nada se ha logrado en relación

y que la distancia entre el gobierno vasco o entre el partido nacionalista vasco y el partido popular el partido socialista de euskadi y upyd se ha ensanchado durante los últimos meses esa es la realidad por lo tanto algo habrán hecho ustedes mal porque ni siquiera han dialogado con estos grupos políticos ustedes se han dirigido a determinadas cárceles para hablar con determinados presos de eta son incapaces de dialogar y no digamos ya acordar con los grupos políticos democráticos de esta cámara en un asunto tan esencial como este por lo tanto fracaso absoluto en lo que se refiere

bajo nuestra opinión no es otra cosa que defensa en todo caso del estado de derecho y de la legalidad vigente fracaso y falta absoluta de consenso la secretaría de paz y convivencia

efectivamente por mucho que el señor iturrate diga que en todos estos planes lo que se pretende es respetar la legalidad vigente es absolutamente falso

la legalidad vigente o vulnerarla o cambiarla pero se obvia lo que dice la actual legalidad vigente y en concreto lo que hemos planteado aquí ciertamente

en varias ocasiones lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos perfectamente establecidos para poder acceder a beneficios penitenciarios

vulnerar la legalidad vigente han obviado la legalidad vigente y han obviado también que ustedes no tienen competencia en política penitenciaria

efectivamente y lo repito que ustedes han estado más cerca de los presos de eta que de las víctimas del terrorismo y desde luego y en todo caso han estado ustedes más cerca de eh bildu que de los grupos políticos democráticos de esta cámara y

parece ser que esto va a continuar así y es ciertamente triste que en un asunto como este ustedes sigan prefiriendo estar solos por lo tanto cómo se resume la acción del gobierno durante todo este tiempo palabrería neolenguaje

reuniones con presos o familiares de presos desatención a las víctimas y rechazo absoluto a consensuar nada ni con el partido socialista ni con el partido popular

ha acertado en una cosa hemos planteado esta iniciativa para recordar qué es lo que dice la ley efectivamente

fundamental recordar a todos los grupos y a todos los gobiernos qué es exactamente lo que dice y la ley que a nosotros nos parece justa lo que tiene que hacerse es cumplirse cumplirse estrictamente para que no haya ningún tipo de impunidad porque además se ha demostrado a lo largo del tiempo que cuanto más y mejor se ha cumplido la ley mejor hemos conseguido los objetivos
de defensa de la democracia amaitzen joan maneiro jauna en fin únicamente agradecer

la firma de esta transaccional esperemos que el gobierno vasco reaccione de manera positiva

con los grupos de esta cámara que le están diciendo claramente que no comparte ni todos los demás programas ni sus actuaciones en relación a la búsqueda
de la defensa en definitiva de la democracia en euskadi eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta señorías está siendo un debate clarificador y se pone de manifiesto que además de que el gobierno vasco no escucha porque ni siquiera está presente en la cámara tampoco lo hace

porque usted dice que el plan está consiguiendo sus objetivos

porque el plan tenía un principal objetivo conseguir el desarme

se ha conseguido algún objetivo con el plan ninguno el segundo objetivo del plan era conseguir lo que ustedes llamaron micro acuerdos se ha conseguido alguno absolutamente ninguno y ya le he dicho no va a ser posible conseguirlos porque algunos no estamos dispuestos como ustedes a renunciar a principios éticos y democráticos básicos no escuchan porque sí efectivamente

porque no aceptaron las sugerencias que por ejemplo mi grupo hizo para incorporar ese plan y no recogieron ninguna no se da cuenta que todos los demás le estamos diciendo

ya se lo dijimos en su momento no se lo décimos ahora mire incoherencia ninguna nosotros mantenemos en la enmienda exactamente lo mismo

tiene que tener como objetivo no conseguir el desarme de eta como está diciendo un día sí y otro también el gobierno sino que tiene que reclamar la desaparición definitiva e incondicional de eta y ustedes

ustedes sabrán por qué ustedes saben que la política penitenciaria

y que los presos tienen que alejarse de la violencia reconocer el daño causado y ustedes en sus planes rebuscan en el diccionario para redactar con palabras amables y rebajar las exigencias que hay que hacerle a los presos de eta

que tiene que haber una memoria de verdad y justicia en el que se recoja con claridad lo que ha pasado en este país donde no se mezclen acontecimientos ni víctimas y usted sabe cuál es el comportamiento y la actitud del gobierno y de los documentos de su gobierno

que nosotros nos empeñamos y conseguimos poner en marcha un decreto para atender el reconocimiento y la reparación a otras víctimas y ustedes se empeñaron en hacer un brindis al sol no negociarlo con el gobierno de españa

otro fracaso en política de convivencia ha habido algún avance ninguno en memoria hay más

ninguno mire este debate y la votación va a poner de manifiesto una cosa que el plan de paz y convivencia solo cuenta con el acuerdo del partido nacionalista vasco y esto debería mirárselo la legislatura pasada había un acuerdo entre pnv pp upyd partido socialista y algunos que después se integraron en la izquierda abertzale

porque no han conseguido que estos señores recorran el camino para acordar con ustedes y se han alejado todos los demás que tenían acuerdo con ustedes por favor escuchen

hagan autocrítica no sean prepotentes escuchen a los demás

muy seria señorías y por eso nosotros una vez más le tendemos la mano al gobierno para que

recomponga el plan de paz y convivencia para que lo haga

y en fin en esta cuestión no merece la pena perder mucho tiempo porque es evidente que no es así es evidente que no es así

ha redactado un plan que no es coherente ni recoge sustancialmente

porque su objetivo era buscar micro acuerdos entre cuatro y para intentar conseguirlo tenían que rebajar los contenidos de ese documento para ver si esos señores se avenían a pactar con ustedes

un año y el portavoz de su gobierno y algunos destacados dirigentes de su partido han tenido que reconocer lo que nosotros decíamos

que no están dispuestos a avanzar porque sabe usted una cosa hay que aprender de la historia estos señores los presos de eta y eta

cuando se mantiene la exigencia y la firmeza eskerrik asko ares jauna

gracias presidenta comparto las reflexiones que han hecho tanto señor ares como el señor maneiro en relación con la cuestión

estaba redactado para hacer lo contrario a lo que se decía

señor iturrate ustedes tienen

una hoja de ruta que tiene dos fases en esta cuestión ese plan

y la otra fase es eludir todos los acuerdos en esta materia con los no nacionalistas eludirlos todos

y su hoja de ruta en relación con esta legislatura del pañuelo naranja está de acuerdo usted señor iturrate con el contenido con el procedimiento que se a puesto marcha están ustedes satisfechos en este momento dígamelo

lo que decía ese acuerdo en relación con su filosofía de desarrollo con el procedimiento al que usted se ha referido y con el momento en el que estamos no le da qué pensar a ustedes

en la comisión y en estas materias que tres grupos parlamentarios hagan esta crítica de esta manera y que la traigan aquí y que acuerden en relación con el sistema no le da a usted que califica como califica esa actitud no cree que hay que hacer algo más con las víctimas del terrorismo y no preocuparse tanto de los presos de eta no se puede entender señor iturrate la actitud obsesiva

la secretaría no se puede entender la convivencia señor iturrate y los presos de eta son conceptos antagónicos e incompatibles

y ustedes los están mezclando pero a nosotros

a confundir por qué no hacen ustedes un acuerdo real y realista con nosotros con el partido popular con el partido socialista y con upyd

hay que currarselo señor iturrate y ustedes

y prefieren moverse en la equidistancia y eso no es gobernar señor iturrate y sí señor se han puesto el pañuelo

más esfuerzos con nosotros esfuerzos que no han hecho señor

lo que usted diga y nada es lo mismo está

a una estrategia que escapa de este parlamento y de la convivencia a usted le gusta eta y su historia y esa ya es reflexión suficiente usted señor arzuaga está

por la vulneración de los derechos humanos que representa eta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko arzuaga jauna zurea da hitza

excepcional que ustedes defienden condenó ayer a siete jóvenes a seis años de prisión por desarrollar una actividad social pública

para verificar después cómo ustedes pretenden aplicar ciertos requisitos legales y legítimos como decía anteriormente que ustedes hoy invocan

ejecución de pintadas responsabilidades a nivel de barrio

ventas de boletos de dicha organización terrorista asistencia

organización de debates reuniones manifestaciones ni un hecho

de esa teoría maldita del entorno de esa teoría maldita de todo una condena soportada única y exclusivamente sobre

y sobre declaraciones realizadas en régimen de incomunicación declaraciones de incriminación testimonios inculpadores arrancados bajo la práctica de la tortura ustedes nos traen aquí ciertos requisitos legales

estricta dicen y me pregunto cómo deben estos jóvenes desvincularse definitivamente de una organización a la que nunca han pertenecido a qué víctimas deberían de pedir perdón con esos requisitos que ustedes

cuál es la responsabilidad civil derivada de sus acciones todas ellas del ámbito político de la actividad social de la iniciativa sectorial juvenil de la actividad

ningún ataque contra bienes o contra personas qué tipo de colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades tendrán que realizar

que permita ayudar a resolver crímenes cometidos por eta pendientes de resolución etcétera me

cómo operarán estos requisitos estrictamente aplicados como ustedes solicitan

de ayer es una vergüenza lo que están haciendo con estos jóvenes es un verdadero escándalo lo que están haciendo con una juventud ciertamente rebelde de este país un atropello

es el carácter político del bucle represivo en el que está inmerso el gobierno del pp ustedes quieren mantener las cárceles repletas

su único proyecto para este país y es eso precisamente lo que les designa lo que los configura como verdaderos enemigos

presidente andrea por supuesto

mi grupo y este gobierno escucha y nos preocupa realmente claro que nos preocupa la situación y nos gustaría poder mejorar los consensos

con quien tiene una decisión tomada y no pretende compartirla con nadie sino imponerla y si no se retira se

y se retira de la mesa y sobre todo cuando se hace desde el prejuicio desde un discurso que no se sostiene en los papeles si desde una perspectiva buenista yo pensaría

pero vamos que sería mejor

la alternativa que sería de que a pesar de que se lo han leído

articulado de antemano que además se produce repentinamente

desde que estaban ustedes en el gobierno y al devenir en el plan de paz y convivencia ni tan siquiera en el momento de las constitución de la ponencia de paz y convivencia en esta legislatura

que cuando el partido socialista propuso la constitución de la ponencia el partido nacionalista presentó una enmienda

fíjese y son muy parecidos a los que usted establece en su enmienda

los trabajos de la ponencia y sabe por qué se retiraron porque el portavoz de su partido dijo que se retirasen que no hacía falta más que decir que se constituya una ponencia para

y votar a favor de la ponencia lo que no sé qué paso después para ustedes que habían estado dispuestos a retirar cualquier exigencia de aquel texto

en aquella ponencia nos obligó a los demás

lo que no entiendo es por qué ustedes pueden no hablar acordar con eh bildu cualquier cosa importante para este país

el modelo de e i te be aunque no tenga nada que ver el que defiende eh bildu y ustedes

en esos momentos estos señores que son partidos no democráticos

se convierten en personas democráticas

y cuando hay que hablar de convivencia resulta que no es que no se puede acordar que me parecería razonable que hasta que no se admita unas exigencias no se acuerde

es que no se puede hablar y además pretende usted que todos los demás dejemos de hablar

que usted y ustedes han dejado estar en el gobierno y no le preocupa tanto presentarse con una cartera llena de consensos porque también le recordaré que los consensos que usted

y en las últimas actuaciones en materia memoria el partido popular y upyd ya se habían descolgado y yo le pregunto qué ha pasado para que firme hoy una enmienda

contraria con quienes defienden exactamente lo contrario de lo que usted ha firmado y ha apoyado en una ley

señor ares no en una proposición no de ley no en palabras no en pájaros y flores en una ley en la que usted se ha comprometido

qué hay de diferencia el problema es que ojalá

el camino ojalá encuentren ustedes el norte ojalá

sosiego para organizarse porque será mucho más fácil

mientras eso no suceda está siendo muy difícil para este gobierno lo intente o no para este partido lo intente o no porque en muchas ocasiones no sabemos ni con quién como usted bien sabe por lo tanto seguimos y vamos a seguir empeñados en el consenso y vamos a seguir hablando

porque no rebajamos nuestras exigencias todavía no nos hemos vuelto

tampoco estamos dispuestos a aceptar chantajes in eternum

no estamos dispuestos a aceptar chantajes hasta el infinito confiamos porque somos perseverantes en este tema porque además

más pronto que tarde podemos llegar a avanzar sobre los principios y sobre los compromisos y sobre las exigencias que tanto ustedes como nosotros hemos

en el suelo ético en el plan de paz y convivencia de la legislatura anterior y confío que así será y entonces espero cuál será la excusa que pongan ustedes en ese momento para no sentarse